buenas tardes señora presidenta muchas gracias señor lehendakari señoras consejeras

tan tempranas recuerdo como

la presidenta de mi grupo parlamentario arantza quiroga

algunas de las cuestiones porque creo que no hace falta inventarse nada

en relación a este tema y porque además reflejan bastante bien la posición del partido popular y

de esta cámara comenzaba aquella interpelación la señora quiroga reproduciendo una frase de quien fuera en su día consejero de interior del gobierno vasco

recordaba una frase que dice lo siguiente en relación a la ertzaintza

y que lucha contra todos los delincuentes estén o no

apoyarse en esta frase para hacer antes de entrar en la reflexión de fondo un breve recorrido de lo que ha supuesto

para nuestra tierra para nuestro país a principios del año mil novecientos noventa en bilbao el agente alfonso mentxaka muere asesinado

con un terrorista de eta era el año mil novecientos noventa posteriormente

una de las cuales dirigía entonces un miembro de la felizmente extinta mesa nacional de herri batasuna continúan pasando los años y la ertzaintza continúa haciendo su trabajo ganando enteros entre la población vasca ganando también en madurez

adquiriendo forma y ganando en profesionalidad como la que hoy podemos disfrutar todos los vascos

es quien por primera vez lógicamente utiliza en nuestro país el video como elemento de prueba ante los jueces como una garantía como un refuerzo también en las garantías constitucionales que le corresponden a cualquier ciudadano también a los delincuentes o a los presuntos delincuentes

desarrolla modelos de coordinación con la policía francesa que han dado

importantes resultados en la lucha contra el terrorismo la ertzaintza

notables como la detención del terrorista pedrito de andoain

ha descubierto fábricas de armas de eta y al mismo tiempo que iba profesionalizando

lo que suponía en esta tierra hacer cumplir el estado de derecho defender euskadi y defender por la tanto a los vascos es entonces y a raíz de esos éxitos y esa implicación

esos éxitos continuos de la ertzaintza cuando la presión es cada vez mayor en la calle

de la kale borroka de agresiones y de palizas como ustedes recordarán el caso más paradigmático lamentablemente más conocido

mikel sagarna en rentería que fue quemado vivo y después apedreado

teniendo que lanzarse a la ría de rentería para proteger su vida desde luego marcada desde entonces pero para entonces la ertzaintza ya había sufrido también

asesinatos entre sus miembros el superintendente juan carlos díaz arcocha y luego posteriormente

y esto no es tampoco una novedad en nuestra tierra de una larga campaña

contra él otra vez más primero poner en la diana para después cometer el asesinato y la realidad

es que quince miembros de la ertzaintza si mis datos no fallan han sido asesinados

su constitución por la banda terrorista eta y lo lamentable es que hoy

todo lo que acabo de relatar y que a buen seguro a cualquier persona de bien le produce escalofríos y desde luego un rechazo frontal treinta

tenemos que afrontar el debate de un documento nacido en el gobierno vasco remitido

en el que se cuestiona de manera indirecta

la profesionalidad y el compromiso con los derechos humanos

y eso estoy también convencido

a la inmensa mayoría de esta cámara hoy venimos a

pero lo que yo vengo a hablar además de defender esta moción es hablar de una falta de sensibilidad

de una falta de sensibilidad que yo estoy convencido que usted lehendakari no tiene estoy convencido que usted no tiene falta de sensibilidad como estoy absolutamente convencido que la señora consejera de interior tampoco tiene falta de sensibilidad

hacia quienes han padecido en general el zarpazo terrorista estoy absolutamente convencido no vengo a cuestionar su sensibilidad

del contenido de ese documento del que políticamente ustedes son responsables que no es lo mismo y es un documento

falta de sensibilidad brutal hacia quienes han padecido en primera persona

no solo los asesinatos de eta sino tener la vida marcada en su propia tierra en euskadi quienes han tenido que hacer su trabajo con verduguillo quienes han tenido que cambiar de domicilio quienes han tenido

para que no les afectara en su vida diaria quienes han tenido

en el tendedero de su casa para que nadie supiera en el barrio en la comunidad que eran ertzainas una falta de sensibilidad

y mujeres vascos que trabajan por nosotros por la libertad de esta tierra y que hoy

que hoy se sienten perjudicados por un documento político que nace desde el gobierno vasco y que cuestiona insisto aunque sea de una manera

su compromiso con los derechos humanos una falta de respeto que se puede corregir que se puede enmendar y que podemos hoy aquí comenzar a corregir

que ha sido demonizado con expresiones como cipayos un cuerpo que ha sufrido como decía antes

de aquellos que no quieren a euskadi y no quieren a los vascos y desde luego no quieren

por qué es una falta de sensibilidad que un documento del propio gobierno vasco

que contribuya a consolidar una cultura de paz convivencia y respeto a los derechos humanos cuando no ha hecho otra cosa

cuando se le pide expresamente que contribuya

por evolucionar en el cumplimiento en sus propias filas de los derechos humanos en nuestra tierra es que hay alguien que se atreve

con datos que no es eso lo que precisamente ya ha hecho la ertzaintza durante todos estos años en su vida ese capítulo

es gratuito sobra y sobra porque genera confusión no solo porque ofende

no solo porque ofende a los ertzainas que están en activo no solo porque ofende a los demócratas de este país

sino porque desprestigia al colectivo de la ertzaintza y en definitiva también cuestiona uno de los pilares de nuestro autogobierno

y cuestiona también su trayectoria es un error incluir

impulsado por el gobierno vasco es un error y los errores se pueden enmendar lo peor

porque como aquí nos conocemos todos afortunadamente yo puedo permitirme el lujo de decir que estoy seguro que el lehendakari

pero lo mismo que digo esto puedo decir que quienes van a aprovechar ese error político del gobierno vasco y del lehendakari para desprestigiar

y eso es lo que usted señor lehendakari y ustedes señores del pnv tienen que corregir

hoy y tienen que empezar a corregir en este debate y con esta moción posteriormente corregir el plan de paz y convivencia

tal y como se nos ha dicho es un plan que está pergeñado y está impulsado para poner en valor la convivencia necesariamente tiene que poner en valor las instituciones que garantizan la convivencia entre los vascos

es una de ellas necesariamente ese documento tiene que construir ayudar a construir un futuro

que dan prestigio y que garantizan el estado de derecho porque sino estaremos dando alas estaremos dando argumentos a los que quieren construir un futuro desde la mentira y desde el convencimiento o propagando la sensación de que aquí todos tuvimos culpa y que tienen la misma culpa el ertzaina que fue asesinado que el que le asesinó

tiene que quedar corregido desde hoy y no podemos permitir que nadie pueda aprovecharse de esas lagunas o de esa falta de sensibilidad

en tolerancia en respeto si nuestra tierra avanza en

poniendo en valor el papel esencial que juega la ertzaintza que ha jugado y que debe de jugar y eso en el documento

no aparece aparece exactamente reflejado lo contrario

gracias señora presidenta señorías comenzaré recordando que para los socialistas vascos el plan de paz y convivencia elaborado por el gobierno vasco es manifiestamente mejorable en su análisis en sus postulados en sus contenidos y en sus fines y así se lo hemos hecho saber por escrito al propio lehendakari

es manifiestamente mejorable como diré en mi intervención lo que hace referencia nosotros queremos un plan de paz y convivencia que se reformule para que sea útil y cuente además

y queremos cómo no que se recuerde el sacrificio el sufrimiento

desarrollando su trabajo en condiciones muy difíciles defendiendo la democracia

porque hay que tener memoria los agentes de nuestra policía han recibido insultos cuando

cuando se les ataca de forma injusta por cumplir con su trabajo cuando no se les permite actuar como policía judicial y se pretende que no detengan a gente recientemente todavía lo hemos comprobado

cuando se sigue amenazando y atacando a sus familias simplemente por cumplir con su trabajo

no puede llevarnos a perder la memoria tenemos que recordar lo que ha pasado tenemos que recordar que en este país

y que también había mucha gente que soportaba esta situación

utilizaba la violencia y el terror para combatir las instituciones democráticas

que trabajaba y desarrollaba su trabajo para defender la paz la democracia

hemos ido desarrollando acuerdos e impulsando políticas

y que aquellos que les daban cobertura y apoyo apuesten por hacer políticas asumiendo la legalidad

aunque tenemos que seguir trabajando para conseguir que eta desaparezca definitivamente y sin ninguna contraprestación es evidente que hay más condiciones y tenemos que

y construir el futuro entre todos pero para hacerlo es necesario que todos respetemos la pluralidad

los socialistas tenemos que decir en esta tribuna alto y claro

las libertades el estado de derecho la democracia los derechos de ciudadanía los derechos humanos

la sociedad vasca tiene que reconocer el buen hacer profesional

a la legalidad y lo que es más importante también respetando escrupulosos protocolos exigentes muy exigentes y que son homologables a las policías más garantistas del mundo por supuesto que siempre se puede mejorar todos los protocolos

mejorar estos protocolos de actuación también lo diré con toda claridad

un error una actuación incorrecta tiene que investigarse esta y depurar las responsabilidades a que hubiera lugar pero no podemos aceptar porque es una tremenda injusticia

algo que literalmente dice que la policía vasca impulsará un proceso participativo de sus agentes desde la base de su estructura para elaborar un proyecto de compromiso social de la ertzaintza por la convivencia y los derechos humanos

con los valores de las libertades los derechos democráticos la convivencia y los derechos humanos no

todo se puede mejorar pero esta redacción es una equivocación

en política es bueno es deseable que se corrijan incluso la literalidad

hemos propuesto una enmienda transaccional con el partido popular que plantea que esta cámara diga algo tan sencillo como esto que el parlamento vasco reconozca y valore el compromiso constante mantenido desde su nacimiento por la ertzaintza en la defensa de la legalidad democrática la convivencia

por supuesto animar a la ertzaintza a seguir manteniendo ese compromiso

y por tanto algo también muy razonable que es que cuando hay una redacción poco afortunada o injusta como en este caso reclamar al gobierno que

para incorporar esos principios a la redacción de un plan que el propio gobierno ha dicho que está dispuesto a recibir aportaciones por lo tanto creo que sería bueno que

entre otras cosas porque señorías se lo debemos a los dieciséis agentes asignados víctimas del terrorismo que defendieron la democracia la libertad y los derechos humanos

se llaman ana isabel francisco javier carlos

juan josé luis alfonso joseba josé luis iñaki ramón josé mari jorge iñaki y miguel ellos y veintidós compañeros más asesinados de las policías locales por supuesto también otros muchos desgraciadamente de la guardia civil y de la policía nacional y de otras policías por ejemplo en francia merecen

que reconozcamos que han desarrollado su trabajo siempre defendiendo a la libertad

y la democracia y que cuando ha habido algún error se ha investigado y ha actuado la justicia o los mecanismos internos en este caso de la propia ertzaintza nosotros pensamos que

ese reconocimiento y que tenemos que tener en cuenta además que

con ese apartado del plan de paz son los propios agentes de nuestra policía

de los agentes de nuestra policía le pido que

porque ustedes mismos mandaron ese documento para que se pudiera rectificar

que hemos planteado porque simplemente recoge esto el reconocimiento de que la ertzaintza ha hecho su trabajo desarrollando plenamente

animarle a que lo siga haciendo y la reclamación al gobierno de que rectifique este apartado

sinceramente creo que con ello estaríamos contribuyendo a evitar una injusticia y además lo que es más importante poniendo las bases para construir un futuro de acuerdos amplios de consensos sobre algo tan importante como es lo que tenemos que hacer en relación con la convivencia y especialmente también reforzando las bases para construir el futuro juntos

esango lituzke no debería extenderme mucho más el tema por mucho que se esfuercen en mantener una lectura torticera interesada

pero si su iniciativa es torticera e interesada señor semper

un trufado de falsedades insidias y calumnias vedadas

con esta iniciativa y con este debate a que algunos deslicen acusaciones graves falsas como las que hemos tenido que escuchar

impunemente durante años en este país usted ha permitido que esta afirmación

manteniendo este debate usted a permitido trayendo este debate falseando la realidad del plan que alguien que encima ha negado esa realidad durante años

el literal de la iniciativa doce del plan de paz y convivencia señorías es impecable y las respuestas del lehendakari en su interpelación no dejan lugar a dudas aquí señor semper no se cuestiona la profesionalidad

ni directa ni indirectamente el plan utiliza los verbos renovar reforzar y profundizar en los compromisos

con los valores libertades y derechos democráticos y en el compromiso y la identificación de la ertzaintza con la sociedad vasca

profesionalidad quien cuestione ese compromiso son ustedes

provocado aquí renovar y reforzar no novar o innovar que no se nace de cero sino que estamos hablando de un concepto sociopolítico diferente decía el lehendakaria en su respuesta a la interpelación

como dar nueva energía a algo transformarlo y el verbo reforzar como engrosar o añadir nuevas fuerzas o fomento a algo y también como animar alentar dar espíritu no veo pro tanto ningún insulto ningún cuestionamiento ningún a la ertzaina en este plan quién cuestiona quién insulta

quién permite que eso se produzca en este parlamento en el día de hoy usted ha citado una serie de éxitos de la ertzaintza todos ellos ciertos y constatables

de los que usted ha citado por no decir todos fueron realizados bajo el impulso y la dirección política del partido nacionalista vasco en la ertzaintza bajo el impulso y la dirección política del partido nacionalista vasco en la ertzaintza el compromiso de la ertzaintza

con los derechos humanos es incuestionable desde su fundación

en cuyo impulso tuvo mucho que ver el partido nacionalista vasco su compromiso e identificación con la sociedad en la que nace y a la que sirven es una de sus principales señas de identidad

y esa identificación lo han hecho amenazando persiguiendo agrediendo asesinando

detrás de un verduguillo en un coche blindado o en comisarías fortificadas biktimak

toca su fin y por tanto cómo no aprovechar esta nueva realidad para renovar reforzar y profundizar en esos compromisos originarios de la ertzaintza como dice el plan

agentes activos a la consolidación de la paz y la convivencia por qué en definitiva entonces ese empeño en excluirles del plan de paz y convivencia

y cuando se habla del papel de la escuela o de los medios de comunicación estamos cuestionando también el papel que ha mantenido la escuela vasca la pública y la concertada

en este país no tenemos por tanto ningún problema en reconocer y valorar

pero no podemos compartir ni permitir que se intente confundir mezclar y leer lo que no está escrito

nosotros preferimos escuchar dialogar y acordar un buen plan un plan que ayude a esta sociedad a pasar la página de la violencia y consolide una nueva historia de convivencia

gracias presidenta buenas tardes a todas y a todos

de acuerdo con la moción planteada por el grupo popular y de ahí que no presentáramos ninguna enmienda efectivamente se podría haber presentado una enmienda y lo pensamos

otro apartado de este plan de paz y convivencia pero puesto que efectivamente la interpelación planteada por el grupo popular se ceñía únicamente a este asunto y a esta iniciativa

era no presentar enmienda y votar a favor de la moción planteada por el grupo popular tenemos una transaccional firmada por el grupo popular y el grupo socialista

nosotros votaremos lo triste es que el grupo nacionalistas vascos no vote a favor de esta transaccional que es impecable en términos democráticos y desde luego merecerá una explicación del propio grupo por qué no vota a favor de esta iniciativa en fin

pueden rectificar y hacernos ver al resto de los grupos que

se ha mantenido siempre y por lo tanto votar a favor de esa transaccional para que no haya ningún tipo de dudas

sesión en aquel pleno de control también realizamos una pregunta al lehendakari sobre la cuestión efectivamente dentro del eje número dos la iniciativa doce habla del compromiso social de la ertzaintza por la convivencia

esta iniciativa dice que los objetivos de la iniciativa son renovar y reforzar el compromiso de la policía vasca con los principios valores libertades y derechos democráticos

la identificación de la ertzaintza con la sociedad vasca y contribuir en este nuevo contexto socio político

convivencia y respeto a los derechos humanos se habla de realizar incluso un seguimiento y una evaluación de sus compromisos

con estos principios a nosotros esto nos parece absolutamente inaceptable y está fuera de lugar en nuestra opinión

ha perdido su compromiso o no lo tuvo con los derechos humanos y tiene que retomar un camino

el grupo popular el grupo socialista upyd y muchísimos

es decir con esta iniciativa y fue lo que yo le dije al lehendakari en aquella ocasión

solo para dar satisfacción a batasuna se le pone en entredicho se duda de su compromiso

irresponsabilidad efectivamente el lehendakari me respondía que estaba sorprendido por las interpretaciones que se han hecho sobre la cuestión

adecuar adecuar ese mismo servicio público a un nuevo tiempo sin el condicionante del terrorismo y añadía ahora tal y como décimos en un nuevo contexto socio político puede contribuir decía

convivencia y respeto a los derechos humanos y lo que le décimos al lehendakari le décimos al grupo nacionalistas vascos es que la ertzaintza ya está comprometida está

convivencia y respeto a los derechos humanos y por lo tanto esta iniciativa sobra de ese plan y convivencia no hay nada que reforzar la ertzaintza ya está comprometida

y el respeto al estado de derecho efectivamente se nos dijo en aquel momento y se nos vuelve a repetir ahora que todos hemos entendido mal todos hemosentendido mal

en aquellos días decía que esta iniciativa nos deja en entredicho es una falta de respeto a los trabajadores

comisiones obreras decía no tenemos que renovar nada que no hemos perdido y esan decía esta propuesta sobra porque ese compromiso

desde el primer día es decir todos entendimos mal al parecer

iturrate menos el lehendakari no sé si menos el grupo de los nacionalistas vascos por lo tanto insisto no es que esta iniciativa sea impecable como dice el señor iturrate en absoluto está fuera de lugar es inaceptable y yo le decía

y lo vuelvo a decir hoy son los cargos públicos de amaiur eh bildu bildu y los dirigentes de sortu los que tienen que recibir cursillos en derechos humanos y en respeto al estado de derecho algo que por cierto ha vuelto a quedar de manifiesto durante la mañana de hoy son los cargos públicos

aquí presentes los que tienen que recibir cursillos y cursillos intensivos en respeto

al estado de derecho no la ertzaintza no los ertzainas por lo tanto tienen ustedes la opción

de corregir de reconocer que se han equivocado y por lo tanto votar a favor de esta transaccional

convivencia y respeto a los derechos humanos y por lo tanto la ertzaintza lo que hay que hacer es darles

darles las gracias por los servicios prestados y poner en valor su trabajo realizado no sembrar dudas que es lo que esta iniciativa ha hecho

ciertamente triste que el partido nacionalista vasco no haya firmado y no vaya a votar esta transaccional en la que este parlamento propone reconocer y valorar el compromiso constante y mantenido desde su nacimiento

este compromiso y que pide efectivamente quiere pedir al gobierno vasco a incorporar este pronunciamiento de la cámara en la redacción definitiva

y convivencia rectifiquen no hay ningún problema en rectificar hay dudas hay muchísima gente que duda sobre lo que este plan propone

rectifiquen no creo que tengan ustedes excusas para poder votar esa transaccional que a nosotros nos parece absolutamente

especialmente gráfica con respecto a la visión que tienen ustedes

y literalmente ha dicho hemos hecho una apuesta por pasar a una nueva era

sabe lo que pasa es que ustedes han hecho un cambio

esta sociedad en el año mil novecientos setenta y ocho tomó una decisión

dotarse de herramientas de convivencia y creó un parlamento dotó

a instituciones forales democratizó su funcionamiento decidimos dotarnos de herramientas para convivir para solventar nuestras diferencias a través de la palabra a través del voto

la inmensa mayoría de los vascos jugó en democracia

que no lo aceptó y que esa no aceptación

y no aceptó que la mayoría de vascos jugáramos en democracia y quiso cargarse la democracia quiso cargarse la convivencia y bien es cierto que consiguió hacernos mucho daño bien es cierto

una policía autonómica integral compuesta por vascos para euskadi y tampoco lógicamente fue aceptada por esa banda de terroristas

y hoy ustedes descubren una nueva era y ustedes deciden incorporarse

y para eso nos dicen la ertzaintza tiene un largo camino que recorrer en derecho humanos falso son ustedes los que tiene un largo camino que recorrer en la aceptación de los derechos humanos y nos dicen a la ertzaintza

legitimación social falso la ertzaintza tiene legitimación social y el problema es verdad

es que ustedes para traer a estos señores en lugar de mantenerse en defensa de la ertzaintza

deciden dar un paso para atrás para contentarles ese es el grave error en el que incurre este documento entre otros oiga mire

o que le preocupa a upyd o al partido socialista o a muchos de sus filas

eso no es lo importante lo importante es que molesta a los propios ertzainas

lo importante es que desde el propio gobierno vasco se permite darle alas a estos señores para desprestigiar a la ertzaintza y para que tengan el coraje

de decir en su enmienda de instar al gobierno vasco a que desarme las actitudes desarme las actitudes actuaciones

y claro que hemos entendido bien lo que dice el documento claro que sí pero sobre todo lo han entendido estos señores que están encantados

y usted en lugar de rectificar que como bien sabe es de sabios

se mantienen les da igual que salvo

se mantienen y están haciendo un grave daño a la imagen a la credibilidad y al ánimo de

y mire no le voy a decir de quién es la cita porque seguro que le va a divertir buscarla pero me parece muy gráfico con respecto a lo que está pasando y dice así a una nación se le conoce por los hombres que le produce

este documento no honra a la ertzaintza cuestiona el papel de la ertzaintza y mire podemos entrar en disquisiciones

o deja de reforzar sabe lo qué pasa que ese documento apela a que la ertzaintza tiene que reforzar no sé qué cosas pero por ejemplo no apela a la izquierda abertzale

y ese es un gravísimo error porque este documento no honra

es un reconocimiento expreso sin necesidad de un procedimiento extenso en el que el gobierno analice no sé qué décimos el resto de partidos políticos a estas alturas el gobierno vasco

en esas estamos en el año dos mil trece señor iturrate de verdad que necesitan una reflexión para que en el plan de paz y convivencia aparezca

en esas estamos pues efectivamente estamos muy mal gracias eskerrik asko semper jauna euskal sozialistak taldearen ordezkaria den

gracias señora presidenta señorías si yo hoy tuviera responsabilidades

o formara parte del gobierno vasco estaría preocupado estaría preocupado

con qué pasión con qué vehemencia el grupo parlamentario de eh bildu

aunque solo fuera por eso ya debería llevarles a reflexionar en qué algo se han equivocado porque si miramos la trayectoria de cuál ha sido el comportamiento de ese grupo en relación con la ertzaintza e incluso

yo por lo menos me lo haría a mirar y pensaría que en algo nos hemos equivocado y que por lo tanto hay que rectificar porque

el plan no recoge solo que hay que renovar y reforzar el compromiso de la ertzaintza con los derechos humanos no

recoge también esto la policía vasca impulsará un proceso participativo de sus agentes desde la base de su estructura para elaborar subrayo para elaborar

y los derechos humanos como si no existiera desde su creación ese compromiso y este es uno de los problemas que hay que rectificar

todos no podemos equivocarnos no pueden equivocarse los agentes de la ertzaintza que han mostrado

no pueden equivocarse los sindicatos de la ertzaintza que han dado su opinión en relación con el mismo no pueden equivocarse algunos de los familiares de víctimas

que al menos conmigo han hablado no pueden equivocarse partido popular y partido socialista al menos cuando estamos planteando algunas sugerencias razonables de lo que tiene que ser la reformulación del plan

es razonable rectificar aquello que ha podido estar mal redactado

estamos haciendo yo les emplazo a que lo hagan porque esta es una cuestión muy sensible y apelo a la sensibilidad de quien hoy es lehendakari que conoce muy bien todo lo que ha ocurrido en relación con la ertzaintza y los debates que ha habido en este parlamento y los procedimientos de unos y de otros en relación

porque lo que proponemos es algo muy sencillo muy razonable que es que se reconozca

la convivencia los derechos humanos las libertades de la ciudadanía vasca y proponemos además en coherencia también con algún apartado del plan

y que por lo tanto el gobierno vasco que ha mandado un plan para recibir sugerencias lo reformule y evite

y solo beneficia a quien todos sabemos y para acabar

la ertzaintza puede necesitar más formación en derechos humanos

formación en derechos humanos en convivencia en protocolos de actuación cuando acceden

y todavía en los últimos años hemos reforzado este papel este trabajo en la academia hay que seguir reforzándolo ningún problema hágase nosotros lo hemos dicho

en la propuesta que hemos elaborado pero permítame

que alguien que viene de un partido de una larga trayectoria democrática como es el suyo ahora asuma los postulados y los planteamientos de quienes nunca han reconocido el buen hacer y el trabajo de la ertzaintza

y menos a sus compañeros de bancada de batasuna porque seguramente algunas cosas usted tendría más visión de conjunto y menos influencia contaminante que desgraciadamente parece que es lo último que ocurre

y por supuesto no puedo admitirle en ningún caso que usted haga referencia

porque es radicalmente falso radicalmente falso ha habido muchísimas denuncias

la inmensa mayoría respondiendo a un manual que muchos de sus compañeros conoce muy bien

y usted ha hecho referencia a tres casos los ha citado sabe cuál es la ventaja de vivir en un estado democrático y de tener

que todos esos casos se investigan tanto internamente como también después la justicia todos ellos dos de ellos

el otro reciente por lo que conozco investigado en estos momentos internamente y supongo que también acabará

por lo tanto le pido rigor le pido que no renuncie a su trayectoria democrática que no renuncie a sus orígenes que evite la contaminación

cuál es el recorrido democrático que pueda tener yo y dónde me tengo que mirar porque es quizás

son distintos pero muy distintos durante muchos años eso lo primero acaba de decir que el compromiso por los derechos humanos se ha ido reforzando estos últimos años los datos creo que son del año dos mil once el responsable en aquel momento era usted veinte sobre dos mil y pico cuando se pasa de uno a dos es el cien por ciento de mejora

en toda esta cuestión es que cuando se plantea que una policía y en este caso estamos hablando de la ertzaintza profundice y se renueve

algo que yo creo que lo tiene que hacer todas se escandalicen tanto se alteren tanto vuelvo al tema

a las nueve veintinueve concretamente porque antes he comentado el caso

comisión interna altercados proetarras en hernani no declarar todo en mayúscula y quien no quiera que no acuda al llamamiento y menos

que se le refuerce su compromiso en materia de derechos y libertades fundamentales entonces

hilo esto con lo que digo que cuando lehen esan dudanean

evidentemente señor semper señorías todos podemos equivocarnos alguna vez

yo no he dicho que todos hayan entendido mal yo he dicho que algunos ustedes no han entendido mal han manipulado

con su iniciativa han manipulado y han retorcido lo que dice el plan no es que han entendido mal es que no han querido entender

atender tampoco a las explicaciones que se les han dado ustedes tenían una idea prefijada porque esto les viene muy bien en su estrategia política

y este plan y este gobierno no quiere marcar las trincheras quiere acabar con las trincheras este plan no mira hacia atrás como decía usted

han manipulado ustedes y han retorcido ustedes y ya veremos si son todos

los que compartimos hay más de veinte aportaciones al plan ya veremos qué es lo que opina se están analizando

si la mayoría de la sociedad como ustedes y el señor

representante de la mayoría social bueno ya veremos cada uno aquí venimos con el apoyo ciudadano que venimos ya veremos la mayoría social porque la sociedad civil a parte de los grupos parlamentarios también han hecho aportaciones ya veremos lo que opinan en relación con el plan en todo caso

ningún paso atrás los planteamientos del partido nacionalista vasco han estado claros desde el inicio desde que impulsó

en solitario la defensa de una ertzaintza para este país siempre y la mayoría de todos estos años liderando políticamente y llevando la dirección de la misma el plan mira al futuro el plan quiere construir

por qué el plan no apela a la izquierda abertzale y sí a la ertzaintza pues claro que apela a la ertzaintza y a los diferentes departamentos del gobierno vasco a las diputaciones forales a los ayuntamientos

a todos los agentes que construyen este país porque este es un plan que mira al futuro que quiere construir y claro y manda deberes y las exigencias a la izquierda abertzale están ya sentadas qué avanzamos repitiendo constantemente

del dos mil trece en este parlamento cuántas veces tenemos que repetir lo mismo

no se puede decir ni más alto ni más claro señor semper lo que opinamos respecto a lo que ha pasado en este país está bien claro y lo hemos dicho

en este país pues no señor semper y usted sabe que no

el tiempo nos va a demostrar cuáles son las contradicciones a las que tiene que hacer frente cada uno y hoy a partir del día de hoy con la toma en consideración de la proposición de ley del instituto de la memoria se verá le agradezco al señor ares esa recomendación

el caso del lehendakari y del partido nacionalista vasco y nos invitaba a reflexionar incluso decía con un tono ciertamente

tienen suficientes cosas sobre las que reflexionar respecto a la posición del partido socialista

por ejemplo de explicarnos de una vez a esta sociedad qué ha sucedido desde marzo de dos mil catorce en el que su partido se ofrecía

eh bildu para retirar cualquier referencia a la ponencia anterior de la proposición no de ley de creación de la ponencia de esta legislatura hasta septiembre de este año qué ha pasado durante estos meses en este país para lo que era posible en marzo no sea posible ahora

qué ha pasado o qué va a pasar para lo que no es posible que en la ponencia paz y convivencia sea posible en la ponencia del instituto de la memoria y la convivencia en fin

cada uno debemos de mirar a nuestro interior y reflexionar sobre lo que tenemos que hacer cada uno ertzaintzari kritikak bai jakina edozein erakundeari kritikak

abertzalearen planteamenduetara señorías no podemos como ustedes comprenderán votar en contra del reconocimiento de la ertzaintza de valorar el compromiso de la ertzaintza en la defensa de los derechos humanos y de las libertades no podemos hacerlo porque sería

durante todos estos años pero lo que no podemos hacer es aceptar que el plan de paz y convivencia parte o establece el principio

por eso vamos a pedir la votación por puntos porque queremos como siempre lo hemos hecho defender

el compromiso de la ertzaintza porque lo hacemos lo hace el gobierno en el plan de convivencia

aunque denunciemos la manipulación y la utilización que de ese tema
han quiero hacer ustedes en el día de hoy nada más gracias eskerrik asko iturrate jauna eta amaitzeko

volvemos a las sesiones ordinarias de esta cámara con un asunto pendiente de resolver

volvemos porque aún no se ha dado solución al problema que los socialistas pusimos en la mesa desde el principio somos conscientes de que hemos conseguido ir avanzando pero a día de hoy hay personas que se plantean todavía si adquirir o no un medicamento que les haya recetado su médico

sin el rigor que exigiría conocer el dato numérico exacto pero sí

que se tienen que hacer esta pregunta y no podemos darles respuestas basándonos en estadísticas aludiendo a que las pensiones medias en euskadi o que somos la comunidad con más jubilados que cobran la pensión más alta

podría hablar de algunas comunicaciones y quejas que hemos recibido en nuestro grupo

sobre las dificultades de algunos pensionistas que nos recuerdan que el tope de ocho euros al mes es por persona

y a veces se acumulan estas demandas de lo que se trata es como décimos de dar soluciones quiero recordar que la moción que se somete a debate es consecuencia de una interpelación que se sustanció el veintiuno de junio la registramos cuando nos quedamos sin respuesta a nuestra principal pregunta qué va a hacer el consejero para impedir que el colectivo

a su grupo al grupo socialista para buscar cualquier fórmula legal que facilitara adoptar las medidas para resolver este problema

que se ha suscrito con posterioridad porque a los socialistas la solución a este tema

y nos preocupa más allá que otras circunstancias era una oferta sincera

se ha concretado en el compromiso mutuo ratificado

unos días después allá por junio el veintisiete de junio este parlamento volvió a pronunciarse sobre esta cuestión

ese día acordamos el siguiente texto arbitrar a la mayor brevedad y en el uso de su capacidad de autogobierno medidas de compensación para todas aquellas personas cuyos ingresos sean inferiores a dieciocho mil euros anuales

y de necesidad desde el uno de julio fecha a partir de la cual se verán afectados por el copago farmacéutico desde ese día

hoy dije entonces y digo hoy que saludábamos el cambio de actitud del pnv que además

en la identificación de las urgencias de esa compensación la de quienes tenían

fueran activos o fueran pasivos aunque luego el consejero

que desdibujó el alcance de este acuerdo y utilizó la lamentable comparación

creo que fue bastante desafortunado porque aunque suene duro hay personas que sí tienen que elegir entre el pan o el fármaco alcanzado pues aquí el acuerdo qué sentido tenía mantener esta moción

impulsamos de hecho habilitar julio para tener las primeras explicaciones del director de farmacia y en esa reunión de comisión anunciamos que en septiembre si todavía no se hubieran dado las soluciones les volveríamos a mostrar la realidad

les está causando un enorme daño porque cuando se trata de derechos con un solo afectado basta para protestar por tanto

como no hemos visto que el gobierno haya resuelto el problema hemos mantenido la moción es verdad que en medio se ha mezclado una nueva tropelía llegado con nocturnidad alevosía y vía boe es el copago de los servicios de farmacia hospitalaria

para que adopte cuantas medidas sean precisas para impedir que este nuevo repago se aplique la próxima semana de hecho fijaremos posición

en contra de este nuevo torpedo contra el derecho a la salud bien nuestro objetivo hoy no es presentar un debate

hoy nuestro objetivo no es otro que la compensación ya a las personas que puedan estar viéndose afectadas en su derecho a la salud

y voy a utilizar el mismo argumento expresado por el portavoz del gobierno vasco para explicar las medidas a adoptar ante el nuevo copago estas fueron razones económicas el nulo beneficio que tiene para las arcas públicas este copago razones sanitarias

y también razones humanitarias por las consecuencias que pueden tener en muchas personas son los mismos argumentos como digo que manifestó el portavoz del gobierno vasco y por eso les urgimos a que resuelven y compensen ya

porque ustedes cuando accedieron al gobierno ya conocían la decisión del tribunal constitucional

ya sé que no les gusta que se lo recordemos pero es así porque ustedes no tenían el plan de compensar de hecho a lo largo de los meses primeros del año se opusieron tenazmente en fin

el señor consejero explicó las virtudes que tenía el nuevo sistema las garantías que tenía el sistema para la aplicación del repago que ponía límites automáticos para evitar devoluciones posteriores

reingresos para no marear al ciudadano y para eliminar el papeleo que no genera valor añadido pero ya le advertimos de nuestras dudas puesto que los datos que figuran en los sistemas informáticos están desfasados

instancias administrativas constantemente como la seguridad social o lanbide bien para certificar que se han jubilado

así que tan virtuoso no puede ser el sistema no puede estar adaptado tan puntualmente pero es que además

al repago va a haber más futuros trámites burocráticos para las determinadas personas así que no lo retrasen

mencionamos esta cifra por ser ilustrativa para demostrar

recuerden cuentan con el apoyo expreso de nuestro grupo pero es que además

en esta cámara se ha opuesto a que lo hagan pocas decisiones podrán decir ustedes que adoptan

con nulo retraso señorías que el copago sanitario es malo para la salud es una obviedad de hecho

que analiza en el informe que muestra cómo el gasto sanitario está directamente relacionado con las posibilidades de sobrevivir a un cáncer

una obviedad no se lo parece a algunos responsables políticos el efecto de los recortes en la sanidad española está siendo analizado ya en numerosos centros científicos

nos hablan del aumento de depresión alcoholismo y suicidios por tanto esto afecta

en estas enfermedades y que no están exentas del copago como otras patologías que por ser crónicas puedan presentar

inmediata es posible el gobierno tardó quince días para hacer una ley

algo que ni siquiera era necesario puesto que basta con que el funcionario lo demande sin embargo llevamos ya camino de los diez meses sin ofrecer una alternativa

los resquicios legales a los que se refería el portavoz del gobierno el otro día y no demoren más estas medidas reiteramos hoy el acuerdo de hace tres meses

con la petición de que el consejero explique cuanto antes a esta cámara cómo lo va a afrontar con qué plazos entendemos que el consejero

en aras a la transparencia que siempre es exigible pero aún más cuando afecta de forma tan directa al bolsillo de los ciudadanos por eso décimos lo que dijimos en junio vamos a ser extraordinariamente exigentes en su cumplimiento y en caso de que el gobierno

volveremos a traer esta demanda cuantas veces sea necesario por eso considero muy oportuna

con el grupo que sostiene al gobierno y que entendemos que otros grupos parlamentarios no tendrán mayor dificultad en apoyar porque aquí se recoge de nuevo el rechazo a las medidas que limitan el derecho a la protección a la salud por otro lado también

y nuestro propio autogobierno y finalmente le insta al gobierno vasco a comparecer en la cámara para que nos adelante

para garantizar que aquellas personas en situación de necesidad y enfermedad

y en situación de riesgo de exclusión social puedan acceder

prescritos por el personal del sistema sanitario vasco y también proponemos que se habiliten las partidas presupuestarias que sean necesarias entiendo que este acuerdo puede ser unánime y en todo caso si no hay alguien que lo apoya por lo menos

efectivamente este es un asunto ya tratado en numerosas ocasiones en esta cámara pero que efectivamente no termina de cerrarse

es la comparecencia del consejero de salud donde nos explique

piensa tomar en relación a este asunto y digo que queda pendiente la comparecencia del consejero de salud porque aunque sí que es cierto que el consejero de salud comparece bastante en este parlamento cosa que hay que reconocer y agradecer si no me equivoco queda una comparecencia pendiente del mismo consejero comparecencia solicitada por upyd en este caso no fue la señora roncal allá por el mes de julio para que se nos explicara

que se nos explicara cuáles iban a ser esas medidas también para que nosotros podamos juzgar si esas medidas pues son jurídicamente impecables o no a nosotros efectivamente nos interesa conocer qué medidas concretas va a impulsar este y de ahí la comparecencia solicitada creo que en pocas ocasiones una enmienda ha resumido

me refiero a la enmienda presentada por upyd nosotros hemos presentado una enmienda de dos puntos que cuando la leo concluyo que es difícilmente mejorable

el parlamento vasco insta al gobierno vasco a destinar el ahorro

que le suponga la obligada porque efectivamente es obligada aplicación del injusto y efectivamente es injusto copago farmacéutico

el que ha dictaminado que disponga que destine ese ahorro a que nosotros proponemos que ese ahorro que ese dinero se

y a los ciudadanos que se encuentran en peor situación y disponen de menos recursos económicos como consecuencia de la crisis económica y de los recortes sociales impulsados por los distintos gobiernos cuyas decisiones nos afectan y obviamente me refiero

el gobierno vasco también ha impulsado distintos recortes por eso digo que la enmienda presentada por upyd me parece impecable y en el segundo punto pedimos nuevamente la comparecencia

nos explique y tengamos conocimiento directo de cuáles van a ser estas medidas por lo tanto el consejero tendrá que hacer un hueco en su agenda para volver a venir a este parlamento y volver a explicar en este caso estas medidas que no se han explicado

por decir más allá de insistir en lo que ya hemos venido diciendo durante todos estos meses que el repago farmacéutico libremente decidido por el gobierno de españa es la penúltima porque efectivamente luego ha habido otras decisión injusta del gobierno de españa

en fin podemos añadir la reforma de las pensiones la congelación del sueldo de los salarios de los funcionarios mientras nos venden que efectivamente salimos de la crisis con falsas mentiras y medias verdades creo que

extraordinariamente cruel está siendo fuerte con los débiles con los fuertes y que al paso que vamos nos dirán que hemos salido de la crisis mientras miles de ciudadanos sufren el desempleo la miseria los desahucios

criticamos los recortes impulsados por el gobierno de españa y los recortes impulsados por el gobierno vasco

y este del repago es un recorte impulsado por el gobierno de españa esto también debe decirse por lo tanto estamos en contra del repago por injusto por innecesario pero que por otro lado es de obligado cumplimiento al gobierno vasco

y aspavientos de los socialistas no le quedaba otra que aplicarlo en fin más allá de cierta demagogia creo que la puesta en marcha del repago ha sido técnicamente impecable y políticamente ineludible

que tome el gobierno vasco sean también jurídicamente impecables y que cuanto antes puedan ser explicadas por este consejero en esta cámara por lo demás pediría la votación por puntos porque algunos de los puntos firmados en esa transaccional

con este acuerdo hemos querido reiterar nuestro

pedir al gobierno que siga defendiendo las competencias sanitarias propias

y que presente en la cámara las medidas que tanto el lehenedakari y el consejero de salud

continua y reiteradamente han anunciado para garantizar que las personas más vulnerables puedan acceder a los tratamientos farmacéuticos

ya existe la voluntad que ahora estamos acordando beraz

el uno de julio del dos mil doce todavía siguen ustedes en el gobierno no había ningún fondo económico previsto por aquel entonces no había ningún fondo económico previsto el partido socialista no ha ampliado el mismo criterio en todo el estado y no se ha adoptado ninguna medida parecida ni en asturias ni en andalucía y supongo que también comerán barras de pan

a lo que ha comentado anteriormente usted la anterior directora de la farmacia también afirmaba el doce de agosto del dos mil doce como se lo he recordado anteriormente que se estaban adaptando

estaba previsto aplicar el copago y en ningún momento se hablaba de medidas compensatorias en ese supuesto

por qué deberíamos pensar los demás que ustedes fueran aplicar medidas compensatorias en este caso

que manejamos reconocemos dicen que el colectivo más afectado son los pensionistas con rentas inferiores a dieciocho mil euros son principalmente los afectados

antes están exentos y ahora pasan a pagar el diez por ciento con topes

que se iban a aplicar que se iban a intentar adoptar una serie de medidas pero que habría que valorar el impacto real que tenía el copago en los colectivos afectados

desde el principio desde el primer momento como sabemos

la normativa los discapacitados los perceptores de la renta de ingresos o de pensiones contributivas los parados de larga duración

las personas en tratamiento derivados de acción de trabajo y enfermedades profesionales y las personas afectadas por síndrome tóxico baina horiez gain

eskatzen zuen baliabide horiek destinar los recursos

a proteger el estado de bienestar y a que el consejero compareciera yo creo que se queda recogido en esta transaccional eta eh bilduren kasuan

ikusita desde luego lo que está claro es que este asunto no es del todo pacífico entre el partido nacionalista vasco y el partido socialista de euskadi

en esta cámara y a pesar de un reciente acuerdo suscrito y según los

ahí están las diferencias me he referido al texto aprobado el veintisiete de junio que no tuvo ningún voto en contra en el que se hablaba de que se compensara a los que tuvieran ingresos inferiores a los dieciocho mil euros anuales

sí que tengo que decir que la iniciativa que hoy se debate en esta cámara la original del partido socialista de euskadi

pero me sorprendió porque se hablaba de compensar a todos los ciudadanos vascos es decir ya veíamos aquí una diferencia con el acuerdo

iniciativa anterior pero a pesar de ese acuerdo y a pesar del pacto ustedes han mantenido esta iniciativa para debate en este pleno hablando de compensación a todos los colectivos

yo le preguntaría a la señora roncal y ateniéndonos a ese texto si

que se compense a pensionistas por ejemplo que antes estaban exentos

y que ahora pagan una cantidad porque eso es lo que decía inicialmente su iniciativa berriro gai honi buruz eztabaidatzen ari gara eta

interpretaciones porque ya el propio consejero y algún otro portavoz al portavoz concretamente del gobierno vasco no hace mucho tiempo

en cuanto a la interpretación del acuerdo de junio o es que al final los dos partidos

en qué colectivo concretamente había que compensar es que

que había que estudiar cómo afectaba el copago fundamentalmente a los pensionistas es que se nos decía también en esta cámara hemos tenido oportunidad de oírlo todos que es un problema que generaba inseguridad que había que buscar la fórmula jurídica más adecuada que era un sistema complejo se nos recordará también que ninguna otra comunidad ha puesto en marcha un sistema de este tipo lo que quiere decir que sencillo no es esto nos decía el propio consejero también

a propósito de esta cuestión también el propio lehendakari en el pleno de política general el diecinueve de septiembre decía que

invito a todos los grupos parlamentarios a que analicen si en relación a la compensación en el copago hay alguna otra en el conjunto del estado español que vaya por este camino

ni de comunidades autónomas gobernadas por el partido socialista yo creo que esto es una evidencia que no solo está dicho por el partido popular sino que lo estamos repitiendo aquí todos los grupos y en este caso lo repitió

con esto a parte del partido socialista que vemos que se mueve en esa constante incoherencia y que defiende unas cosas cuando gobierna y otras cuando no

teniendo las pensiones más bajas pues le vendría muy bien que estableciera algún sistema

no habla de compensación allá donde gobierna en este caso en andalucía con las pensiones más bajas y decía que al partido nacionalista no le veo muy entusiasmado con esto de la compensación y quizás sí que le veo realmente entusiasmado y al consejero le veía muy entusiasmado

declaraciones también tengo que decirle con los nuevos criterios del copago

es que también usted consejero decía que con independencia de visiones apocalípticas por los datos que se desprenden de la edición de farmacias un poco las personas en activo que precisan tomar fármacos de manera continua la mayoría de las prescripciones corresponden a analgésicos antinflamatorios y antibióticos tampoco parece

a las rentas de aquellos activos o pensionistas con rentas superiores a cien mil euros

cámara ya me he referido al partido socialista plantean fórmulas de compensación

pues no hacen nada también decía el consejero que no entendía por qué el mismo partido no defiende las misma posturas aquí o allá bueno es que estamos señor consejero

legislatura y parece que esto también es algo consustancial al psoe al partido socialista y

y estaban viendo cómo poner en marcha el nuevo copago porque lo estaban viendo la directora de farmacia hizo unas declaraciones el doce de agosto de dos mil doce diciendo que estaban adaptándose quizá se estaban adaptando porque el consejero bengoa el anterior consejero de sanidad

que era partidario del copago que el actual sistema era insostenible en el tiempo y hablaba que tenía que ser una decisión nacional eso decía el señor bengoa al poco de tomar posesión de su cargo sí que es cierto luego mantuvo una postura distinta

hacer oposición simplemente al gobierno de mariano rajoy a lo que también se vio

a favor del copago como hizo en numerosas declaraciones al principio de la legislatura decía que cuando ustedes gobernaban iban a poner

como también lo evidencian numerosos testimonios no establecieron ninguna fórmula de compensación ni para las rentas inferiores a dieciocho mil euros ni para todos

de compensación en ningún sentido y lo que es más no dejaron previsto ningún fondo económico para

ya lo dije y lo vuelvo a repetir somos el país que más consumimos medicamentos

son tres mil setecientos setenta toneladas envases los que se tiran al a la basura

y cuarenta y cinco millónes de envases sin abrir esos son los datos señorías por lo tanto el decreto del dieciséis

quería y ha pretendido establecer neurri zehatzak bideratzen

etorkizunean egonkorra izateko y por eso se establece nuevos criterios

que tienen en cuenta la renta la edad y el grado de enfermedad se trata de arbitrar un sistema más justo equitativo y solidario y protegiendo precisamente a aquellos que más están sufriendo la crisis económica como son los parados de larga duración pensionistas hay que recordar que los pensionistas por primera vez van a pagar en función

en función de la renta y no todos están exentos como pasaba anteriormente digo que también

estos son los colectivos exentos y los enfermos crónicos que a todos nos preocupan también hay que recordar aquí

que cuentan con un gran número de fármacos con la consideración en medicamentos de aportación reducida

más equitativo más solidario los parados de larga duración que antes pagaban el cuarenta por ciento con este sistema no pagan los pensionistas antes estaban todos en la misma situación ahora se tiene en cuenta la renta y sí quisiera recordar que

a la vez que se ha utilizado estas medidas concretas que buscan la sostenibilidad del sistema como decía el señor bengoa al principio de la legislatura anterior que no se estableció ningún copago sanitario

por estar hospitalizado por hacerse una prueba diagnóstica

farmacéutico existía ya lo que seha hecho es redistribuir los criterios voy acabando señora presidenta aportan más los que más tienen y los que menos tienen no aportan nada

lo avala el auto del tribunal constitucional cuando no levanta la suspensión del decreto del gobierno vasco cuando dice que hay que preservar y mantener un mismo modelo de prestación farmacéutica para todo el sistema nacional

está claro que el copago ha tenido un efecto disuasorio a tenor cifras de medicamentos caducados y tirados a la basura

en el país vasco los datos del país vasco ahí están en una respuesta parlamentaria también respondida a este grupo y ahí están los datos

en julio y en agosto más de uno millón gracias a estos ahorros

más avanzados fármacos innovadores un total de treinta y ocho medicamentos desde dos mil doce señores del pnv y ahora sí que voy acabando señora presidenta

que no al nuevo sistema del copago pero luego lo aplican y luego cuando hablan de compensación les surgen muchas dudas dicen que están pendientes de la sentencia del tribunal constitucional

que hay que analizar la situación para ver el impacto el lehendakari hablaba de prudencia yo también me pregunto que por qué

por qué no lo han hecho desde el principio y por qué no tienen también la valentía de hacerlo extensible a todos los colectivos

como las que he dicho anteriormente cuando son los criterios que ha establecido el gobierno del partido popular y no nos vendan tampoco como bondad el limite automático del copago cuando otras comunidades y alguna del partido popular

por lo tanto no critiquen tanto las reformas del partido popular porque gracias a las bondades y a las reformas del partido popular

los pensionistas ahora contribuyen en función de la renta al pago de los medicamentos y los parados de larga duración que antes pagaban el cuarenta por ciento

puesto que usted aquí ha expuesto en esta cámara que está deseando que andalucía y asturias

para tener recursos suficientes para iniciar compensaciones al copago

que facilite un concierto económico que permita disponer de recursos económicos suficientes a estas comunidades autónomas

recursos suficientes para hacer una compensación al copago farmacéutico en fin

se defendió en esta sede parlamentaria su oposición al copago

en sede parlamentaria debatimos acerca del copago hubo un acuerdo unánime

en rechazar el copago y que todos quedamos de acuerdo que la sostenibilidad del sistema sanitario

en la financiación mediante impuestos jamás mediante copagos que como se ha visto a través de esos ahorros que ustedes mencionan son ridículos a lo que es el presupuesto global del departamento de sanidad

y uno en agosto pero ahorros para quién son gastos que han hecho los ciudadanos ahorros para el sistema sanitario público pero es porque los ciudadanos

señalando que además de pagar impuestos para sostener el sistema sanitario haya que continuar desembolsando para poder tener acceso a los medicamentos

como usted misma ha reconocido

el copago no buscaba la financiación del sistema ni la sostenibilidad solamente buscaba el efecto disuasorio

en cuanto a los colectivos que dice usted que ya vienen protegidos

porque los parados de larga duración no tienen automáticamente resuelto el tema del copago resulta que además han tenido que haber

para poder tener acceso a la gratuidad de los medicamentos de modo que las compensaciones o las exenciones al copago son menos de las

español que era uno de los más baratos de europa eficiente naturalmente que manifiestamente mejorable pero desde luego ni el copago ni el ataque a la

ciudadanos en situación administrativa irregular facilitan en absoluto

lo que usted ha mencionado podemos estar de acuerdo pero no es objeto del debate de hoy hoy

podemos sostener no podemos no estamos en esa situación el tribunal constitucional nos ha exigido el cumplimiento obligado de la puesta en marcha del copago nos lo ha exigido el tribunal constitucional en democracia además de tener ideas hay que cumplir las leyes

nos ha recordado cuál era nuestra obligación por lo tanto hoy

el debate es qué políticas compensatorias podemos tener en este momento aquí teniendo en cuenta un criterio de renta nunca ni de edad ni sexo ni religión ni condición de activo o pasivo laboral

determinar el reparto de esfuerzos a la hora de aportar ingresos porque todos los que nos sentamos en esta cámara hasta el uno de julio pagábamos el cuarenta por ciento pretende usted propone

ese diez por ciento porque pasamos a un copago del cincuenta no creo que usted pretenda que el gobierno nos devuelva ahora

que tenemos de obligación nosotros defendemos la seguridad jurídica no queremos que en un futuro los afectados deban devolver el dinero que se les dé de la compensación

que es rechazar la medida injusta ineficaz del gobierno de españa y que esto no impida a ningún ciudadano vasco

a los fármacos que le recete su médico por tanto

señora garrido lamento mucho su posición una vez más

porque defender la política del señor rajoy es imposible ya lo ha oído usted escuche y sobre todo mire a los ciudadanos que el señor rajoy como se ha dicho aquí ha implantado una política
pero también además ineficaz desde el punto de vista sanitario económico y social nada más y muchas gracias eskerrik asko roncal andrea mistoa

para que den en el blanco zarete zuek sois vosotros

los que posibilitan que los torpedos den en el blanco y ese blanco

es el sistema público de calidad universal y equitativo y es lo que estáis desmantelando

bai eskerrik asko presidente anderea la verdad señora roncal no he entendido cuando se ha dirigido a la señora ubera hablando de compensar a todos

se habla de que se compense a todos los ciudadanos vascos que en la mayor brevedad posible en uso de capacidad de autogobierno se establezcan medidas de compensación para todos los ciudadanos vascos por lo tanto

es muy clara un sistema más equitativo más justo y más solidario señora roncal parados de larga duración sin prestación antes cuarenta por ciento ahora cero antes cuarenta por ciento ahora cero sí o no a estas medidas

sabe cuál es una de las palabras claves del real decreto aprobado sostenibilidad y sabe usted por qué es la palabra clave sostenibilidad porque el sistema nacional de salud

esa es la deuda del sistema sanitario sí la que dejaron ustedes eran expertos en dejar deudas y déficit en andalucía lo que lo pongo de manifiesto es para evidenciar la contradicción del partido socialista

no predica con el ejemplo precisamente en andalucía donde ustedes y están las pensiones más bajas yo no estoy diciendo que no se aplique el decreto no no no intente ver donde no ni leer donde no tiene que sino que ustedes no son no son coherentes porque allá donde gobiernan no predican con el ejemplo y miré torpedo es que los laboratorios de farmacia y proveedores de tecnologías sanitaria en andalucía no se les pague y tengan que denunciar a la junta de andalucía

y que la demora media es de cuatrocientos treinta días cuando la consejería de salud y bienestar andaluza tiene una deuda de once millónes de euros pero de qué nos están hablando

cuando dejan de gobernar claro el sistema nacional de salud era insostenible igual quizás por eso la señora pajín hablaba de establecer un copago simbólico claro no le dio tiempo a definir

simbólico y señores del partido nacionalista vasco
isildu mesedez la verdad es que me reconocerán que un poco de papelón con este asunto ya les ha tocado
a tenor y leyendo bien las declaraciones efectuadas por el consejero de sanidad en esta cámara desde luego lo que sí parece claro es que no le venía mal las medidas establecidas en el decreto del gobierno del partido popular quizás por eso

un ahorro en el gasto farmacéutico en la respuesta también que ustedes han

al julio de este año hay un ahorro de seis millónes o en agosto de cinco millónes

en función del autogobierno tal tal tal pero luego aplican el decreto en su literalidad les viene muy bien que los parados también los parados vascos que antes pagaban el cuarenta ahora no paguen nada

ustedes reconocen las bondades de este decreto so las ha reconocido el consejero

apelaban a la seguridad jurídica apelaban a que este tema puede ser

están más contentos de lo que parece con el decreto y con las medidas del partido popular a nivel nacional

es gracias a las medidas valientes de un gobierno como es el gobierno del partido popular eskerrik asko

adibide gisara le queremos recordar al partido popular que su reforma de las pensiones no tiene ninguna legitimidad en euskal herria aquí no tiene ni la mayoría política ni la mayoría social ni la mayoría sindical

y el partido socialista habéis declarado estar en contra de la reforma

de que paséis de las palabras a los hechos nosotros os seguimos invitando a que aprobéis las iniciativas que hemos puesto encima de la mesa pensamos que son de justicia que son las que necesitan los pensionistas y las pensionistas de este país y que además podemos entre todos y todas porque es posible hacerlo y es justo sobre todo es justo pentsio osagarria